es muy importante en estos momentos que desde todos los sitios incluida desde esta comisión se ayude a conseguir

lo que sucedió y a remover cualquier tipo de obstáculo que pueda haber para que podamos llegar a saber qué es lo que verdaderamente sucedió

un poco de humanidad un poco de humanidad no pido más que eso

beste bat izan behar du eta hemos tenido acceso al auto de acusación del

que ha aparecido en prensa en él se establece con absoluta nitidez dónde decide intervenir la justicia penal y en qué otros ámbitos decide no hacerlo una disección de bisturí que nos indica de manera quirúrgica qué trabajo realizará la justicia y qué otro

para que lo acojamos nosotros ese otro trabajo deberíamos realizar

efectivamente la investigación penal reconoce que no entrará a determinar ciertas negligencias cometidas en la aplicación de protocolos tales como las cometidas por el responsable del bunker que reconoce que no registró las tareas de reposición y precinto posterior de las bolsas de

habían sido utilizadas el juzgado deja fuera de la causa penal el por qué no se subsanaron las alteraciones en la asignación de armas ni entran en la sanción disciplinaria que entiende que deberían imponerse

llevó a cabo alguna reunión de coordinación entre mandos para planificar aquel día de la que además se asegura se levantó acta no concretará si como se dijo se realizó una inspección ocular para determinar los daños materiales causados por la intervención y sus conclusiones el juzgado de instrucción determina que no valorará

no analizará si se le dio cuenta y si conocía el operativo

ampliar el foco de la actuación judicial vía recurso pero parece meridianamente claro que esos son los parámetros que

la causa penal y cuáles son esos otros parámetros que quedarán fuera de ella y que por ello se deben de dirimir en una investigación de otra índole de análisis de funcionamiento de orden operativo de razón política

que la intervención penal lo determinará objeto de interés y que deberían de analizarse en esta ponencia que proponemos habría que determinar por qué concurrieron negligencias tales como que no se diese aviso de carga si el tiro se realizó siguiendo el protocolo con rebote o en posición de firme si se respetaron las distancias

de proporcionalidad habría que analizar el papel que realmente tuvieron los mandos policiales en la transmisión de ordenes si estas eran correctas o si eran contradictorias entre lo que unos veían en la plaza y lo que otros interpretaban o querían interpretar desde la sede policial

a que había un tumulto o había otros intereses previos vinculados a la entrada en aquella plaza sería necesario concretar todo lo que tiene que ver con la cadena de mando que participó en los hechos desde quienes actuaban a pie de calle pasando por quien emitía ordenes en el terreno quien ordenaba entrar con todo desde la sede policial en deusto hasta determinar el papel que jugó

de esta que hoy día además se identifica según algunas informaciones periodísticas con un candidato

qué se incluyó en él y que no si ha existido o no

sus compañeros y la propia consejería para que ese expediente no se lleve a cabo y para que no se de información o se dificulte la misma en el caso

policiales que emitieron las ordenes estuvieran sujetas a protocolo

quién redactó quién avaló políticamente esos protocolos

evidentemente estos permiten que se produzcan tragedias como

en este ámbito sería necesario dirimir cuál es el papel que tuvieron tanto el consejero como el viceconsejero en la gestión de la crisis su papel en la forma de difundir la información en la confusión creada incluso valorar la declaración pública del señor posteriormente diciendo que se sentía engañado subordinados el papel de la consejería en comparecencias posteriores en este parlamento la verificación de si al aportar información errónea se actuó de manera

en la adopción de medidas cautelares contra quienes se sabían

a este caso la verificación de si tal y como se anunció se realizaron modificaciones en ciertos protocolos o se adoptaron decisiones definitivas en el empleo

a raíz de este caso o si no se hizo así mismo y sin duda a otro nivel sería oportuno verificar la actuación de la actual consejería sucesora en la gestión de este caso si las medidas cautelares que se adoptaron apartando a seis ertzainas de sus puestos de trabajo venían marcadas

o como se aseguró tenían otra razón de ser en qué profundidad y con qué extensión

que la consejera aseguró se habían producido concretamente en los protocolos setenta y dos setenta y tres y setenta y cuatro mediante su cotejo con los anteriores protocolos deberíamos de analizar si cuestiones como el empleo de material antidisturbios por lanzamiento de proyectiles de goma que se aseguró sería sustituido

o si por el contrario está definitivamente y en todo caso y en toda circunstancia abolido y en su caso por qué material ha sido sustituido nos decía manu cabacas no es justo creo yo

con un pelotazo que todavía aún utilizando esas pelotas cuando están prohibidas según dice la prensa por europa creo que eso se tenía que haber ya quitado esas pelotas que ya se han visto

que a partir del uno de julio todos los agentes uniformados

ese hecho a día de hoy se reconoce que todavía no es una realidad si informaciones tales como la promoción al jefe de aquel operativo

a cargo de la consejería hecho que genera desde mi punto de vista un horrible agravio comparativo con las expensas económicas que asume la familia de la víctima en el procedimiento si se han realizado actuaciones que vienen a dibujar

un cierre de filas entorno a este caso por las razones sean de presión interna o de cualquier otro interés galderak

señor lehendakari iñigo cabacas resultó muerto el nueve de abril de dos mil doce como consecuencia del impacto de una pelota de goma lanzada

tras una serie de sucesos ocurridos tras un partido de fútbol lo primero que queremos hacer es

y volver a mostrar nuestra solidaridad con los padres

sus allegados y sus amigos nos encontramos ante una desgracia mayúscula que esperamos no

de dos mil doce se dieron un cúmulo de circunstancias fatales

mala fe y mucho menos que hubiera intención de matar como en algunos círculos se ha venido a plantear se unieron dramáticamente una serie de circunstancias incluida una que nosotros consideramos fundamental que es la mala suerte obviamente

y es lo que nosotros pedimos pero que haya margen de mejora en las actuaciones policiales no quiere decir que haya responsabilidades políticas

no atribuibles a los mandos políticos y sobre todo que se dieron un cúmulo de circunstancias lamentables

la mala suerte creemos que el gobierno vasco reaccionó desde el inicio rápidamente y mostró buena voluntad creemos también que este desgraciado hecho por decirlo de alguna manera le podría haber ocurrido a cualquier otro gobierno de hecho

ya le sucedió en el pasado se trata evidentemente de que no vuelva a ocurrir se trata de limitar o minimizar los riesgos y tomar las medidas necesarias para ello entre ellas la sustitución

al objeto de evitar en la medida de lo posible que hechos tan lamentables vuelvan a producirse en nuestra opinión más que la creación de una comisión de investigación lo que queda ahora es que siga trabajando la justicia y ya digo impulsar las medidas necesarias para que estos hechos

o al menos para minimizar los riesgos el día

se debatió este asunto en este parlamento en aquella ocasión se aprobó una enmienda transaccional que no recibió el voto contrario de ningún otro grupo fue una enmienda de transacción pactada entre el partido socialista de euskadi el partido popular upyd ya digo que salió aprobada y ningún grupo político votó en contra de ella en fin esperamos que en esta ocasión haya un consenso
tan amplio como entonces en la defensa de los argumentos planteados en aquella enmienda gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta buenos días a todos

en otros debates el día cinco de abril del pasado año fue un día trágico lo que debería ser una noche de celebración

en una noche que acabó conmocionando a todos los aficionados y a toda la sociedad

ocasiones en esta cámara y se lo dije a los padres de iñigo cuando comparecieron aquí mismo desde el partido popular queremos volver a reiterar a sus padres a su familia y a sus amigos nuestro pesame nuestras condolencias y nuestra solidaridad

que te puede pasar en tu vida creo que es algo muy muy difícil de superar

será suficiente porque con ninguna iniciativa se va a poder llenar ese vacío de la pérdida de iñigo sinceramente creo que lo ocurrido aquel día

ya que una noche de celebraciones no puede finalizar siendo una noche de luto desde el minuto uno lo dijimos hay que averiguar todos los hechos qué es lo que sucedió

que un joven que va a celebrar una victoria de su equipo después muerto hay que averiguar lo que sucedió y tomar todas las medidas para que algo así no vuelva a suceder y también lo dijimos desde el minuto uno este es un tema tan grave

porque creemos que ello nada beneficia al conocimiento ni de la verdad ni de la justicia hacer política de un tema tan doloroso consideramos que no es ni procedente ni ético porque nosotros compartimos con la familia y con toda la sociedad

justicia pero en los tiempos y con los procedimientos que están legalmente establecidos volvemos a reiterar en la necesidad de que sean depuradas todas todas las responsabilidades pero seguimos manteniendo que esa depuración debe realizarse

en este sentido desde el grupo popular creemos que en un tema como este de esta entidad y gravedad que está judicializado nosotros el parlamento no podemos realizar también

de realizar juicios paralelos y sí de asegurar que la justicia con la máxima independencia sin condicionamientos ni internos ni externos

se está tramitando el proceso judicial para determinar si hubo responsabilidades y el grado de las mismas este juzgado decretó secreto de sumario posibilidad que recoge nuestro marco legal y que tiene precisamente por objeto evitar

que pongan en riesgo el éxito de la investigación y la averiguación de los hechos de la causa a pesar de este secreto de sumario todos hemos conocido que desde este juzgado se ha imputado a cuatro agentes que existe un recurso para que esa imputación

la investigación pormenorizada con el fin de recabar las pruebas que contribuyan a fijar si existe causa penal respecto a los sucesos acontecidos es la justicia la autoridad judicial la que tiene que fijar el relato de hechos la que tiene los hechos probados la que tiene que determinar si se actuó o no con proporcionalidad aquel día si se siguieron o no los protocolos si se cometieron errores o no una justicia a la que nadie se puede oponer a acudir y a declarar una justicia en la que los testigos tienen que decir la verdad justicia que cuenta con todos los datos y que aquellos que no disponga puede solicitar desde este grupo parlamentario por ello entendemos que se debe respetar a esta justicia

es que se colabore activamente con la justicia que se le ofrezca toda la información a su alcance

con todos estos elementos se determinará cómo sucedieron los hechos se determinará el relato probado a partir del cual se exigirán

las disciplinarias y las políticas y se exigirá a todos aquellos que las tengan sean como ejecutores o como planificadores de las actuaciones

por parte de los jueces si existen responsabilidades penales y si las hubiere las consecuencias de las mismas

será tiempo de continuar con la tramitación de los expedientes disciplinarios que procedan en suspenso en este momento por la aplicación de las leyes y de los reglamentos policiales

que con un proceso penal en marcha el procedimiento interno queda a expensas de la resolución judicial en la iniciativa se pone de manifiesto y aquí también se ha dicho que la investigación judicial es una excusa para no llevar a cabo una investigación interna

nuestro grupo no comparte en absoluto esta afirmación porque tal y como establece el artículo noventa y uno de la ley de policía la resolución definitiva de los procedimientos disciplinarios

firme vinculando además a la administración la declaración de hechos probados que contenga por lo tanto al margen de que haya finalmente responsabilidades penales se podrá exigir responsabilidades disciplinarias porque estas puede haberlas y así lo hemos dicho en otras ocasiones aunque las penales no existiesen pero habrá que esperar a que recaiga resolución firme porque además los hechos que contengan esa resolución

para exigir las responsabilidades disciplinarias y después si en su caso las hubiere también habrá lugar para pedir las responsabilidades políticas nosotros lo dijimos como he dicho antes desde el minuto uno cuando la justicia actúe cuando hable si hay lugar a responsabilidades políticas el grupo popular será el primero en exigirlas pero no compartimos la necesidad en este momento de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas consideramos que la existencia de una comisión de investigación en este momento no ayudaría ni a la verdad

porque como decía para depurar estas responsabilidades lo primero es conocer de forma probada los hechos que sucedieron aquella noche y esa prueba esos hechos probados volvemos a reiterar una vez más es la justicia las que los tiene que determinar y es de ese relato de la justicia cuando se podrá saber qué errores se produjeron si se produjeron y quiénes en su caso son los responsables de los mismos porque ya lo digo y lo acabo de decir desde el grupo popular

en nuestro caso las políticas pero desde luego habrá que hacerlo en su momento y con la intención desde luego de hacer de que se depuren las responsabilidades y de que hechos como estos no vuelvan a suceder

quiere la justicia y la verdad la verdad que establezcan los hechos de las resoluciones judiciales y la justicia

de este parlamento no es establecer la verdad y la justicia sino exigirla de quien como digo en nuestro estado de derecho tiene

y por ello queremos poner de manifiesto que se deben respetar los tiempos porque la sucesión de hechos que se dieron aquella noche es verdad que algo tuvo que suceder

sucesos como estos son muy muy puntuales por eso es importante determinar qué falló y por qué falló

que se depuren todas las responsabilidades que se vea qué falló y por qué falló y que se tomen las medidas para que esto no vuelva a suceder

la propia ertzaintza estoy segura que es la primera interesada en ello

es nuestra policía creo que son injustas las manifestaciones tal y como ha dicho el señor maneiro que en esta cámara hemos tenido que oír de que la ertzaintza aquel día actuó con la intención de hacer daño puede cometer errores errores de los que tendrá que responder en su caso pero su forma de proceder es llevar acabo su labor respetando las leyes y los reglamentos

lamentables como este no pueden poner en cuestión la trayectoria de una policía que ha sido ejemplar en la defensa de los derechos y libertades de los vascos termino como empecé

para que sucesos como los acontecidos no vuelvan a repetirse porque la vida y el proyecto vital de un joven como iñigo no puede volver a truncarse

creemos sinceramente que iñigo y su familia se merecen conocer la verdad

se merecen sobre todo justicia pero para esto debemos dejar de los tribunales

egun on guztioi antes que nada quiero expresar como ya lo he hecho en otras ocasiones la solidaridad del grupo socialista con los padres

como también he dicho en otras ocasiones los socialistas hemos estado muchas veces muy cerca del dolor y hemos perdido a gente muy querida por lo que somos extremadamente sensibles

dicho esto quiero anunciar que el grupo socialista nos vamos a oponer

que ocurrieron el cinco de abril de dos mil doce y que tuvieron como desgraciado desenlace

junto con sus abogadas comparecieron ante esta cámara para dar a conocer el desarrollo del proceso judicial en marcha

entre otras cosas tanto lospadres como la abogada resaltaron su preocupación por el transcurso lento que estaba siguiendo dicho proceso y pusieron sobre la mesa concretamente la señora

que de alguna manera paliara la lentitud de la justicia los diferentes grupos dimos nuestra opinión

se mostró claramente a favor de la creación de dicha comisión e inmediatamente registró una proposición no de ley que hoy debatimos el trámite de enmiendas finalizó el veintiocho de mayo

debatido esta iniciativa desde ese día se han desarrollado once plenos ordinarios

de eh bildu hubieran considerado que esta iniciativa era de urgencia o de interés solo tenían que haberla incluido en alguno de esos plenos

como el cambio de la fiesta de la comunidad autónoma la creación de una ponencia sobre el modelo de producción energética o la solidaridad con el pueblo catalán por citar solo tres de los veintiuno temas que han traído cámara en estos once plenos que me he referido ustedes los portavoces de bildu son los únicos responsables de que esta iniciativa haya hibernado en este parlamento durante más de cinco meses y esto señorías a nosotros nos crea serias dudas sobre las intenciones del grupo eh bildu al respecto

consideramos que no les preocupa la búsqueda de la verdad lo que realmente les interesa es el ruido mediático el beneficio político y la manipulación del dolor porque quiero recordar

estaba supuestamente pensada para compensar la lentitud del proceso judicial abierto en relación con este caso y ahora resulta que la creación de esta comisión que era tan urgente

está dando ya sus primeros resultados y se conocen ya una serie de imputaciones insisto a ustedes lo que les interesa es un juicio paralelo a pesar de haber escuchado a la señora goirizelaia en este parlamento decir que las mayores garantías para llegar al fondo y delimitar todas las responsabilidades es la instrucción judicial minuciosa

ahora que la justicia está realizando sus primeras conclusiones es crear un instrumento que se contraponga y contradiga si es posible lo que determine la justicia lo que quieren es una herramienta

no de ley ustedes en esa argumentación ya han decidido que los responsables políticos han ocultado hechos y pruebas han sentenciado que hay responsabilidades políticas

por eso no han tenido el más mínimo interés en activar la comisión la han tenido dormida hasta que ustedes han considera que es oportuno contrastar con lo que vaya diciendo la justicia lo que les interesa una vez más

deslegitimarla y cuestionar su carácter de policía democrática al servicio del país y de sus ciudadanos y ciudadanas lo que pretenden con esta propuesta es ir contra un consejero de interior y su equipo

a una organización terrorista en las calles de nuestros pueblos y ciudades esto

porque les interesa desprestigiar porque les interesa que esta cuestión se alargue toda la legislatura a ser posible

sobre la actuación del departamento de interior el anterior en manos del partido socialista y el actual departamento de seguridad con distinto signo político porque todavía

la deslegitimación y desestabilización de las instituciones democráticas de euskadi y nosotros no nos vamos a prestar a ese juego aquí no hay nada que ocultar ni existen oscuros pactos para ocultar nada como tratan de hacernos creen ustedes

ha sido precisamente la transparencia el elemento conductor

que pidió comparecer en este parlamento cuando tuvo conocimiento de los hechos que compareció

medidas para evitar que estos hechos pudieran producirse en el futuro que paralelamente inició una investigación interna y que puso todos los datos de esa investigación en manos de la justicia

este mismo consejero el que era consejero volvió a comparecer

que está dispuesto a hacerlo cuantas veces haga falta porque no tiene nada que ocultar señorías

porque la hemos sufrido en carne propia y también sabemos que las víctimas no podrán entender nunca por qué son víctimas es difícil

y ustedes señores de bildu deberían tomar nota de lo que está ocurriendo deberían darse cuenta de que hay decisiones judiciales que pueden no ser entendidas que incluso pueden ser dolorosas

sin perjuicio de la opinión o crítica que nos merezcan estas decisiones es recodar el valor de los tribunales

y confianza en que todos los que estamos en esta cámara al menos quienes no hemos llegado a la democracia ayer queremos que se sepa la verdad

en conclusión votaremos en contra de la proposición de eh bildu porque estamos firmemente convencidos de que la comisión de investigación que pretenden

absolutamente nada más de lo que aporte la justicia muchas gracias eskerrik asko

ante unos hechos que provocaron la mayor crisis de confianza en la ertzaintza por parte de la sociedad vasca a lo largo de toda su historia

nos exige a todos un especial esfuerzo por aclarar lo sucedido depurar las responsabilidades que pudieran derivarse y para reparar en la medida de lo posible el daño causado en primer lugar a la familia cabacas pero también

pasados seis días de los hechos el entonces el viceconsejero de seguridad

y nombrando instructor en ese mismo acto dejaba en suspenso la investigación

desde ese mismo momento la investigación de los hechos era asumida por la jueza titular de este juzgado según consta a este parlamento

el atestado y sus sucesivas ampliaciones las grabaciones tanto de las llamadas al ciento doce

grabaciones de las cámaras cercanas al lugar de los hechos y todos los documentos policiales relacionados con el caso además se puso a disposición del juzgado número diez de bilbao a cinco ertzainas destinados a este caso

la voluntad y el compromiso de la actual consejera de seguridad con el esclarecimiento de los hechos ha sido claro desde su llegada al departamento y así lo ha comprometido también

de favorecer la mejor investigación posible para el esclarecimiento de los hechos

y poder atenernos a las conclusiones de la misma y en definitiva poder depurar responsabilidades hace ya unos meses y raíz de la filtración parcial

el departamento apartó a seis de los agentes participantes en el operativo de sus funciones operativas habituales mientras algunos a partir de esa filtración parcial

comenzaban ya a dictar sentencia en base a esas grabaciones

de aquel cinco de marzo se modificaron los protocolos de actuación y las instrucciones en relación con las investigaciones internas el registro y uso del material antidisturbios la identificación visible de los ertzainas y lo hemos podido comprobar

durante el año dos mil trece recientemente hace escasas semanas hemos conocido la imputación de cuatro de los ertzainas que participaron en el operativo mientras continúa la instrucción del caso

en marcha durante ya más de diecisiete meses en la que se tiene especial acceso a todos los hechos evidencias y testimonios cuando la investigación avanza es cierto que a menor velocidad de lo que nos gustaría pero avanza cuando acaba de cambiar la calificación de varios ertzainas y ya hay imputados en la causa tiene algún sentido abrir ahora

va a aportar algo a la verdad del caso y es más es realmente la búsqueda de la verdad el objetivo que se pretende con esta propuesta

nosotros creemos sinceramente que no una comisión parlamentaria no aportará

que no aporte la investigación judicial no va a poder investigar ni con la dedicación ni con la objetividad ni con la cualificación con la que lo haga la instrucción penal es más la actuación de la comisión parlamentaria necesariamente se vería comprometida por el juego de mayorías y minorías el interés partidario y los prejuicios de los grupos políticos y de eso tenemos buena prueba en este parlamento en fechas no tan lejanas

el mayor amigo de la verdad es el tiempo y su más encarnizado enemigo

y nosotros queremos conocer la verdad que se haga justicia y se repare el daño causado en la medida de lo posible

hoy volvemos a reafirmar nuestro compromiso solemne con la verdad en lo que a nosotros respecta en lo que al partido nacionalista vasco respecta y a este gobierno

y se compartirá con la sociedad vasca la responsabilidades que se deriven del relato de los hechos se exigirán en todas sus extensiones penales económicas y políticas ese ha sido desde el principio el compromiso del partido nacionalista vasco y lo es también de este gobierno verdad

antes que nada resolvamos una falacia sobre la presunta incompatibilidad de la vía penal con otras vías

o políticas la señora llanos mencionaba el artículo noventa y uno punto cinco de la ley vasca de policías sobre el régimen disciplinario pero solamente nos leía la mitad de este

dice la iniciación de un procedimiento penal contra miembros de la policía del país vasco no impedirá la instrucción por los mismos hechos de la información previa o expediente disciplinario correspondiente con la adopción en su caso de la suspensión provisional de los expedientados o de las demás cautelares que procedan no obstante la resolución definitiva será una vez recaída sentencia firme vinculando a la administración a la declaración de hechos probados repito adopción de medidas cautelares se han adoptado

tanto a los presuntos perpetradores como a los que han cometido negligencias como ha la garantía de que los protocolos si se estaban utilizando mal tendrían un responsable pero si los protocolos se estaban utilizando bien

no es incompatible con la propia ley en la mano es cuestión de mera voluntad más aún

que dejarán pelos en la gatera sin resolver y que desde mi punto de vista desde nuestro punto de vista se retomar en sede parlamentaria para seguir profundizando y para seguir dirimiendo la verdad la justicia en torno a esos hechos hoy la respuesta que

no será a favor o en contra de este parlamentario no será a favor o en contra

de eh bildu será a favor o en contra de establecer la verdad será a favor o en contra de la necesidad de sentar justicia en toda su extensión hoy estarán a favor o en contra de la oficina del ararteko que hablaba de irregularidades y de la necesidad de resolverlas mediante un control político hoy estarán a favor o en contra de amnistía internacional que apuntaba la necesidad de un monitoreo externo en este caso que

en órgano parlamentario pero sobre todo estarán a favor o en contra

a favor o en contra de lo que la familia nos reclamó aquí

la sociedad horrorizada con este caso que demanda una respuesta y no actitudes escapistas actitudes como los tres monos que no oyen no ven no dicen señor unzalu que no quieren oír no quieren ver no quieren decir hoy actuarán a favor o en contra

se debe exigir y hacer todo lo posible todo lo posible de acuerdo

se debe averiguar lo que pasó y segundo tomar todas las medidas todas las medidas el señor unzalu dijo somos los más decididos adalides

nos exige a todos y a los responsables públicos mucho más un especial esfuerzo un especial esfuerzo que es lo que se reclama en esta proposición no de ley no nos mueve más interés que determinar lo que sucedió por qué sucedió y quién tuvo la responsabilidad material y política de que sucediese

un mando o los responsables políticos que redactan los protocolos no es función del parlamento establecer la verdad y la justicia de verdad de verdad eso se ha dicho desde este atril de verdad hoy dirimimos qué

mandan los agentes que blanden una escopeta se autorigen por sí mismos

quienes dan las órdenes operativas concretas o están a su vez sometidos al poder político mandan los políticos

o manda lo accidental manda la mala suerte manda un cúmulo de circunstancias lamentables manda un hecho puntual manda un error

manda el azar de la trayectoria de una pelota de goma manda un proyectil mortal de itinerario incierto

y que comparezcan ante esta ponencia eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

precisamente por lo doloroso

desde este grupo queremos ser contenidos en el debate no queremos hacer política

que es una gran tentación no hacerla con usted porque oír a alguien como usted

de si los proyectiles mortales se pueden justificar o no si no queremos

ciegos sordos y mudos con comportamientos que vulneran derechos oírle decir eso a usted y mantener la serenidad para no convertir esto en un debate partidista es ciertamente

difícil pero voy y vamos a intentar hacerlo mire ustedes

con este tema no quieren la verdad y la justicia

no la quieren ustedes lo que quieren es hacer un juicio político que no es lo mismo que exigir responsabilidades políticas

lo dijimos desde el minuto uno vamos a ser los primeros que las vamos a exigir los primeros pero no es lo mismo exigir responsabilidades políticas

un juicio político a quien en su momento estaba al frente de la ertzaintza y un juicio político a quien

pero sobre todo usted a quien quiere hacer un juicio político es a la ertzaintza

y creo que tenemos que ser todos los grupos responsables

y con la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos creo que todos tenemos que ser responsables porque afirmaciones como las de que vamos a impulsar los nuevos valores o que en el plan de paz se establezca

con la democracia no es bueno y pone en cuestión a la propia

que vuelvo a repetir en su procedencia normal habitual

ha respetado la ley los reglamentos y los protocolos

quizás tengamos que hacer una reflexión para ver si esos protocolos

los que se tienen que aplicar y creo que medidas ya se han tomado es que usted aquí ha venido a exigir una serie de medidas que ya se han tomado y que ya se han debatido en esta cámara las pelotas de gomas las comparecencias de responsables políticos se ha debatido

y yo usted ha dicho la frase que yo le dije

y lo reitero la reitero averiguar lo que pasó

es ante la justicia y tomar todas las medidas para depurar las responsabilidades por este hecho gravísimo y desde luego tomar todas las medidas

pero eso no quiere decir tomar todas las medidas

que además no están dirigidas le vuelvo a reiterar a conseguir la verdad y la justicia sino hacer

además ha intentado usted hacer política diciendo que aquellos que nos oponemos

nos estamos oponiendo a la transparencia a la verdad y la justicia nos estamos oponiendo

no vamos a votar en contra de una iniciativa que a nuestro juicio no persigue el fin que usted ha dicho aquí no lo persigue persigue hacer un juicio político que precisamente

se consiga averiguar la verdad y para que se consiga hacer justicia esta comisión de investigación lejos de contribuir iba a entorpecer ese objetivo y por eso nosotros a lo único que votamos en contra es

nosotros vamos a votar a favor de que se sepa la verdad vamos a votar a favor

vamos a votar a favor de no sustituir el proceso judicial por la politización del mismo por responsabilidad

que el mejor favor que podemos hacer a quienes reclaman verdad justicia y reparación es

en estos momentos dejar que concluyan las decisiones de la justicia

por un debate político que es el que se trasladaría

al rechazar su iniciativa no vamos a votar en contra de nada vamos a votar a favor de todo lo que yo le he dicho muchas gracias eskerrik asko

iñigo cabacas que hemos definido como la crisis más grave en la historia de la ertzaintza se han producido y antes de que

muchas modificaciones en la normativa y en los

porque se han explicitado en sede parlamentaria recientemente en esta legislatura la instrucción setenta y dos

supervisar operaciones policiales especialmente problemáticas y que tuvimos ocasión de comprobar en el caso de los incidentes de anoeta la instrucción setenta y tres sobre uso de material antidisturbio que fueron limitadas algunas prácticas distancia de tiro intensidad de la bocacha protocolos de registro y salida y entrada de material y asignación de armas a cada ertzaintza

pelotas de goma se utilizan en países europeos incluso en países que son paradigma de la policía de cercanía de la policía de proximidad como gran bretaña por ejemplo

de policía de proximidad en gran bretaña se utilizan están

las pelotas de goma las mismas que se utilizan aquí la instrucción setenta y cuatro de abril del dos mil trece que recoge toda una nueva normativa

sobre el uso del nuevo lanzabolas la orden de uniformidad general y distintivos que introduce el número de identificación personal en el pecho y que está ya en uso en muchísimos de los uniformes y en todos los de los agentes

en todos los de los agentes de la brigada móvil en el primer trimestre del dos mil trece

en marcha los nuevos lanzapelotas material más ligero y menos lesivo con un programa de formación en arkaute por el que han pasado dos mil trescientos agentes

señor arzuaga y usted lo sabe perfectamente quedan definitivamente restringido su uso a la brigada móvil

y bajo autorización y hemos visto además durante estos meses que es posible otra forma de actuar lo hemos comprobado

con una investigación inmediata por parte del departamento lo hemos visto en el caso de las murallas humanas en las que se puso a prueba y se quiso provocar la acción de la ertzaintza y la ertzaintza respondió de una manera ejemplar

de la falacia de la incompatibilidad entre la investigación judicial y el parlamento

y yo le voy a decir la verdadera falacia es que usted hable

es buscar la verdad en este caso aquí detrás de esta proposición no de ley no hay más que una utilización de una estrategia antigua

y le voy a decir más como ha dicho el señor unzalu desde el día tres de mayo

presentó registró la iniciativa hasta hoy han pasado más de seis meses y medio han pasado veintiuno iniciativas pero es más

porque ustedes tienen veintiuno parlamentarios se ha dirigido a algún portavoz

propuesta ha preguntado tan siquiera el sentido del voto no a usted no le importaba concitar mayorías en torno a esta proposición porque lo demás o esusted un negligente si le importaba y no ha hecho nada o realmente

que es desgastar porque ustedes

ustedes ya han establecido su verdad y ya han dictado su sentencia solo por una filtración

de radio ustedes usted señor arzuaga ha llegado a afirmar en sede parlamentaria que la orden de entren con todo lo que tenemos

usted ha dicho eso ustedes han establecido ya sus conclusiones han dictado su verdad y su sentencia para qué quieren una comisión de investigación entonces y es más le diré cuál ha sido la experiencia de este parlamento en cuanto a comisiones de investigación

juicios mediáticos indefensión de los comparecientes falta de respeto a la presunción de inocencia utilización partidaria de los tiempos algún cargo público como la

ni aparecer en ninguno de los procedimientos a lo largo de esos meses sobre el seguimiento al final del caso en los tribunales

bajo los mismos objetivos de búsqueda de la verdad y lo que es peor bajo la presidencia de un miembro

por lo tanto insisto esta comisión de investigación no busca la verdad busca utilizarla en una estrategia de desgaste

denunció en el caso de la última comisión de investigación la indefensión de los comparecientes en sede parlamentaria

es a favor de la verdad es a favor de la justicia y es a favor de la reparación no es a favor de la manipulación yo le pido señor arzuaga que dejen de manipular el dolor para hacer ventajismo político nada más gracias

lehendakari hoy

muy importante que afecta de una forma tremenda a un sector delicado el sector de los servicios y de los bienes culturales un sector que está boqueando si me lo permiten por una subida desmedida

que se les aplica el gobierno del partido popular subió hace un año el iva a los productos culturales excepto el libro desde el ocho por ciento hasta el veintiuno por ciento actual

en el único país de la eurozona que ha decidido que la cultura y la compra de un artículo

el más alto de europa donde oscila entre el cinco por ciento de francia hasta el trece por ciento de grecia o portugal que por cierto son países rescatados y sin embargo

mucho más bajo que el nuestro es además un problema de concepto especialmente

como al tipo general o como un tipo reducido como un tipo especial

para el gobierno del partido popular parece que es un sector como los demás y le aplica el tipo general el señor rajoy aplica esa subida desorbitada sin preocuparse por la situación del sector

ya se sabía que el consumo cultural disminuía por la crisis económica se retraía el gasto familiar

de los ayuntamientos que son quienes más contratan espectáculos

cambios profundos en los medios de distribución de producción y de creación

que a su vez reflejan una evolución muy importante en la manera en la que acceden las personas a la cultura

ha marcado una tendencia de disminución en el uso de las artes escénicas del cine y de los espectáculos musicales que tiene una incidencia especial en euskadi aquí está disminuyendo de forma apreciable el número de espectadores y los ingresos de las artes escénicas desde dos mil nueve tendencia que se acentuó en dos mil doce año en el que se subió el iva y esto es importante la tendencia se acentúa con la subida del iva

el número de espectadores de las artes escénicas en conjunto en el país vasco disminuyó en cuatro años entre dos mil ocho y dos mil once un catorce coma cincuenta y tres por ciento y sin embargo disminuyó un dieciséis coma cuatro punto y medio más en un solo año

un dieciséis coma ocho por ciento de espectadores y entre dos mil once y dos mil doce un quince coma veintitrés por ciento prácticamente lo mismo en cuatro años que en uno podría seguir pero creo que está claro

la crisis había colocado al sector contra las cuerdas y el señor rajoy le dio la puntilla

trece puntos nada menos que un ciento sesenta y dos coma cinco por ciento en vez de protegerlo

porque las instituciones tienen la responsabilidad de apoyar no de sangrar la cultura ya lo dice la constitución los poderes públicos promoverán y tutelarán

todos tienen derecho pues muy bien el pp promueve el acceso a la cultura haciéndola más cara es la inversión de la lógica

porque al no ser un impuesto proporcional su incremento afectará proporcionalmente más a las personas con menos recursos así que la democratización de la cultura el acceso de todos a la cultura para otro día de todas formas deberían ser más responsables porque el desfallecimiento de la cultura produce pobreza intelectual y el deterioro del tejido cultural no se regenera automáticamente el día siguiente de inyectar dinero cuanto más tiempo pase más difícil será

los más vulnerables son los más creativos los más alternativos son los que abren nuevos caminos en este caso

son la siembra de la cultura que apunta si se deja morir a la vanguardia

también es una fuente de ingresos muy importante representa

del empleo en españa y un cuatro por ciento del pib pero llevamos ya dieciséis meses

y estamos en situación de emergencia el sector está devastado

son sordos al clamor del mundo de la cultura que muestra su desesperación públicamente tampoco escucha el partido popular a los partidos que como el socialista advirtió del desastre desde el principio y sigue exigiendo

que se restituya el valor original del ocho por ciento el gobierno está solo también en esto y sin embargo no quiere reconocer la evidencia de los datos

a mí me cuesta creer que la decisión se apoyara también como dicen algunos artistas en la venganza contra las críticas públicas que algunos de ellos han hecho a algunas políticas del gobierno sería una irresponsabilidad pero cada vez parece más que es así cuando el ministro montoro arremete contra el cine español aludiendo

como causa de la grave situación del sector claro que luego ha tenido que retractarse pero la intención es manifiesta en cualquier caso pretendían recaudar más y lo han logrado pero la pérdida de la actividad es mucho mayor que la subida obtenida en la recaudación

se recaudaron cuatro millónes de euros más en el último trimestre de dos mil doce

la caída de la actividad y el sector fue de trescientos veintiocho millónes de euros un veintidós por ciento cuatro veces más que la caída de las bases imponibles

hemos perdido empleo y hemos perdido disfrute cultural

en el mismo sentido un informe de la federación de empresas de teatro y danza el único que hay prospectivo hasta ahora indica que los seis primeros meses de aplicación de la subida del iva

un veinticuatro por ciento es decir dos coma ocho millónes de espectadores menos

lo que se deja de recaudar en el impuesto sobre sociedades

supera con mucho el incremento de recaudación por la subida del iva también está en juego la supervivencia del sector

hace más caro los bienes y los servicios culturales frente alternativas como el acceso

no hay más que problemas y el sector está al límite se necesita una política cultural de estado con políticas de estímulo y protección como es una ley de mecenazgo entre otras medidas de la que tampoco se sabe nada pero con urgencia se necesita lo que el grupo socialista propone hoy aquí primero

reponiendo el tipo reducido original dos establecer el tipo reducido del iva para las actividades culturales

proponer y defender en el seno de las instituciones de la unión europea

armonizado con un tipo máximo por debajo del diez por ciento en cuanto a las enmiendas hay una del grupo nacionalista que creo muy alejada del interés del sector

de la comunidad no es el debate de hoy pero en cualquier caso quiero recordarle a la señora gorospe

sobre los modelos y plazos de ingresos y que la tendencia marcada por directivas europeas es armonizar los impuestos indirectos en toda la eurozona ese principio está también en el concierto para entre otras cosas garantizar

en todo el territorio del estado sin que se produzcan efectos discriminatorios por eso las juntas generales por eso digo por cómo está pactado el concierto económico por eso

para definir los impuestos directos pero no los indirectos que es lo que pretende usted hoy aquí y como le digo creo que no tiene sentido dentro de un mismo estado

o sí en cualquier caso los ajustes financieros que se hacen

no nos perjudica precisamente yo tomaría con tranquilidad y rigor este asunto mire yo le propongo que volvamos al tema de solucionar el problema real acuciante y gravísimo que tiene el sector cultural en gran medida

aplicado con éxito por el anterior gobierno socialista el bono cultura es difícil encontrar una actuación del gobierno que haya sido tan aplaudida y sobre la que se perciba una aceptación tan generalizada el bono tiene un efecto multiplicador muy eficaz de los fondos públicos el pasado ejercicio por cada euro público empleado generó un consumo de dos coma seis euros

implicaron compras por valor de uno coma cincuenta y seis millónes de euros en productos culturales además del efecto

y esto incide directamente en lo que debatimos hoy en la necesidad de apoyar a un sector que está atravesando una crisis muy profunda el gobierno del señor

sin poner nada que lo sustituya no se entiende por qué perjudican ustedes al sector cultural

que por parecer el bono cultura les parece bien porque el señor bilbao le ha enmendado la plana al lehendakari y dice que lo va a implantar señora gorospe para qué pide usted decidir sobre el iva si no usa la competencia que tiene para ayudar al sector o es simplemente que el pnv no tiene política cultural y cada uno anda por libre

están para bromas y en cuanto a la propuesta de la diputación foral de bizkaia que ha anunciado una especie de bono cultura

que todas las características de esa oferta porque entre otras cosas no distingue entre tipos de establecimientos en general de todos los que venden productos culturales y eso incluye por ejemplo

lo cual no incide como incidía el bono cultura del gobierno directamente sobre la protección

vasco de pequeños comercios de pequeñas librerías de las de barrio que tenemos que ayudar

señor reyes debo decirle que lo que no

lo que no tiene relación es que venga aquí a hablar del bono cultura usted ha presentado una iniciativa en la que se insta al gobierno de españa a tres puntos concretos y usted nos ha soltado reprochando al grupo nacionalista vasco lo que hemos presentado

que ver con el objeto de la iniciativa que usted ha presentado porque de lo que se trata es de establecer y modificar los tipos de gravamen

indirecto y que no tenemos capacidad normativa propia sí tiene que ver directamente y viene a hablarnos de otras cuestiones

nada que ver con lo que usted presenta pero que desde luego sí que pueden ser objeto de debate si quiere de otras iniciativas no reproche a otros lo que usted está haciendo no obstante para que no tenga ninguna duda desde luego el gobierno vasco el gobierno del lehendakari urkullu sí que tiene política cultural

del gusto del sector aunque a usted no le guste usted nos ha dicho que son las juntas generales a las que le corresponden y que tienen capacidad normativa claro en modelos y plazos

indirectos que es lo que nosotros en nuestra enmienda de adicción solicitamos porque si así fuera

en el marco europeo respetando la armonización nosotros las juntas generales las instituciones de los territorios históricos

directamente podrían intervenir sobre el tipo de gravamen

al sector cultural sin tener que estar rogando y suplicando que el tipo que se aplique sea otro fíjese si es importante

zentzu honetan agertu izan direlako es tiempo de bajar impuestos

del pp es la del bajar impuestos quiroga

o cuando todo el mundo está ya viendo la posibilidad de ir a una rebaja de impuestos

si es tiempo de bajar impuestos será más aún de bajar un impuesto que afecta negativamente a un sector económico como el cultural

gracias presidenta estamos de acuerdo con la iniciativa planteada por el grupo socialista de hecho ya hemos votado a favor de ella

la ha planteado el partido socialista y nos parece correcto que haya sido así

hemos votado a favor de esta iniciativa idéntica nos parece correcta y de ahí que no hayamos presentado ninguna enmienda votaremos por lo tanto

se apuntan datos interesantes en relación a la actividad económica y recaudación y también señala algo que nosotros consideramos fundamental

dificulta el acceso a la cultura y supone un freno y una disminución objetiva de la asistencia de los ciudadanos a eventos

importante en su intervención el señor reyes ha apuntado también otros datos interesantes que nosotros compartimos y a partir de ahí se propone que este parlamento inste al gobierno de españa a reconsiderar la subida del iva para bienes y servicios culturales

y a proponer y defender en el seno de las instituciones de la unión europea

por debajo del diez por ciento yo digo que estamos de acuerdo nosotros hemos criticado

en el mismo congreso de los diputados la medida tomada por parte del gobierno de españa y ya el día seis de junio de este año upyd realizó en el congreso de los diputados en la comisión de cultura una pregunta

preguntando entre otras cosas sobre los objetivos fiscales que se pretendían conseguir con esta medida posteriormente el siete de julio upyd

de la aplicación de esta subida teniendo en cuenta que este sector en españa genera doscientos cincuenta punto cero empleos

por la aplicación de esta medida puestos de trabajo y recaudación se han visto reducidos e incluso nuestro propio eurodiputado

realizaba una pregunta concreta a la comisión europea la pregunta decía lo siguiente siendo conscientes de formar parte de una comunidad cultural europea ha valorado la comisión la posibilidad de redactar una directiva armonizadora de la fiscalidad cultural argumentando que las industrias culturales tienen un especial significado en europa

así como de la cohesión local y regional y por ser este uno de los sectores más castigados por los recortes estas han sido alguna de las iniciativas que nosotros hemos planteado además de otras la cultura es uno de los pilares del desarrollo humano y una parte imprescindible del proceso educativo

como de la educación informal en el momento de crisis actual además

haber aumentado o mantener ese aumento del iva para los bienes y servicios culturales

de un tipo reducido a un tipo general equiparándolos a otros bienes como el alcohol el tabaco los cosméticos o los servicios de peluquería nos parece que es un grave

de convertirse en uno de los focos estratégicos del gobierno para mejorar los niveles de desarrollo de su ciudadanía y además se destruye la

estamos de acuerdo con la iniciativa del grupo socialista ya hemos votado a favor en otras partes de españa hoy también aquí volveremos hacerlo obviamente votaremos en contra de la enmienda de totalidad

entendemos que el objetivo debería ser armonizar la fiscalidad en europa ir hacia una política fiscal común y única no fraccionarla

si es que se llega a votar votaríamos en contra de esa

muchas gracias señora presidenta la verdad es que estoy un poco sorprendido por cómo se está desarrollando esta iniciativa

porque que a nosotros planteen reconsiderar

nos parece bien porque esperamos además que el gobierno de mariano rajoy reconsidere no solo sobre este sector sino sobre todos los demás

establecer un tipo reducido del iva para las actividades culturales pues no se sorprende más porque para más de la mitad de las actividades culturales

yo creo que deberíamos de centrar el debate en lo que realmente estamos hablando y lo que realmente se nos ha planteado se nos ha planteado

a unos empresarios concretos de unas actividades concretas

ni a la producción ni a nada semejante se ha subido el iva del precio de las entradas que el empresario

o no y aquí al parecer los señores empresarios de este sector en concreto han decidido repercutirlo íntegramente en los consumidores

a este sector en concreto hay que hacerle un favor a estos empresarios de este sector en concreto hay que hacerle un favor

y los que fabrican coches más y aquí nadie plantea

y son varios miles de personas más y creo que el producto interior bruto que se tiene sobre todo en el país vasco en el sector del automóvil más importante sin embargo no veo a ninguno de los grupos que apoyan entusiásticamente esta medida

como concepto me parece bien que desde el partido socialista o desde el partido nacionalista vasco

que es el momento de bajar los impuestos porque nosotros lo hemos dicho pero sin embargo ustedes nos han ofrecido un pacto fiscal para subirlos a todo el mundo y a todos los sectores

un poco sorprendido porque nuestra propuesta fiscal sí era bajar

pero en donde hemos podido hacer cosas para que la reforma fiscal

pues lo hemos intentado y algo hemos conseguido señor reyes

es que cuando se actúa de vocero de parte porque la federación de empresarios del teatro hace un informe que dice esto es un desastre que es contradictorio

y que es contradictorio con lo que usted nos ha dicho porque claro es bastante contradictorio que se nos diga que la caída ha bajado mucho

porque usted mismo reconoce que llevaba tres años bajando el número de asistentes básicamente porque los ayuntamientos habían dejado de subvencionar obras

asistentes a actos porque hay menos actos así de claro señor reyes y usted lo sabe y lo sabemos todos

lo cual quiere decir que algo aquí es un poco contradictorio es que resulta que se recauda más incluso hay más asistentes

y cuando las obras de teatro son buenas sean españolas o no le voy a decir que

y en fin creo que el sector cinematográfico británico sí que es mucho más potente que el español y cuando se nos cita al francés

y que lo lleva hasta el veinte por ciento y por lo tanto también se paga un veinte por ciento sobre ese precio de la entrada en francia entonces vamos a ver si nos centramos un poco en lo que se hablaba y en lo que se planteaba yo le iba a decir

hasta votamos a favor porque en fin decirle al gobierno de españa que reconsidere

en todos pero claro viendo el discurso y que luego encima se nos diga que es que por lo visto

de críticas políticas de determinado sector si vamos a ir por ese camino pues a lo mejor le tengo que plantear usted que usted nos plantea esto para pagar servicios prestados o de qué estamos hablando

pues lo hacemos si el debate es ese lo hacemos si el debate

que no está muy boyante que nunca ha sido muy boyante pues podemos entrar y podemos hablar

o probemos a hablar de bonificaciones que ya hay de más de cien millónes de euros al año a ese sector en concreto de producción cinematográfica y teatral

por ejemplo que es bastante más de lo que se recauda por todos los conceptos del sector pero podemos hablar si quiere hablamos de eso

sus contradicciones también son fantásticas porque usted ha hecho una enmienda de adición

hay un punto del partido socialista que pide

pero bueno si los países europeos se ponen de acuerdo por fin en alguna medida concreta

estaremos de acuerdo pero es contradictorio que usted vote en el punto tres

para toda europa y en el punto cuatro diga usted que quiere poner el que le dé la gana

porque usted cuando está diciendo yo quiero tener capacidad normativa distinta

entonces claro decir en el punto tres que queremos un tipo uniformizado en todo europa y en el punto cuatro decir pero yo quiero poner el que me dé la gana

en cualquier caso le voy a recordar que en el pacto de mil novecientos setenta y nueve en materia fiscal se cumplió más que escrupulosamente lo que no le puedo admitir ni permitir es que venga a esta tribuna a decir que en materia de concierto económico

en ningún tipo de impuesto aquí haya ningún pacto incumplido porque le voy a recordar y se me está acabando el tiempo que el actual concierto económico que tenemos que es el que mayor capacidad nos ha dado a lo largo de la historia en todos los impuestos

es indefinido se hizo gobernando el partido popular con mayoría absoluta y gobernando en el gobierno vasco un señor ibarretxe con el cual en fin

ni con sus políticas ni con sus planteamientos con él personalmente no teníamos evidentemente nada en contra pero no creo que responda a que es que el pnv

le voy a recordar que ese mismo gobierno vasco dejó tirados a los tres diputados generales que habían ido a firmar

concierto económico en diciembre de aquel año que vencía y el gobierno vasco se negó a hacerlo

dos meses después porque jugaba a otra cosa a lo mejor jugaba

por eso le digo que en materia fiscal no venga a darnos lecciones ni a ponerse medallas porque en este aspecto el partido nacionalista vasco pocas tiene que dar

friburgo sobre derechos culturales se basa en la declaración universal de derechos humanos de tal forma que los derechos culturales

la declaración es uno de los instrumentos clave para los derechos culturales que reúne y hace explícitos los mismos que ya están incorporados de forma dispersa en numerosos instrumentos internacionales

botereari eusteko ez baitira komenigarriak y así es dar los pasos necesarios hacia la soberanía como instrumento y contexto para la justicia social y política también lo es para la justicia cultural que es de lo que estamos hablando hoy nos liberaríamos de la carga lastre negación e imposición

la clase y el régimen político que gobierna en el reino de españa y en este caso el iva cultural también es uno de esos lastres

y la propia en particular porque el gobierno de madrid como he dicho anteriormente no quiere cabezas pensantes ni activas que creen realidades diferentes y cuestionen el sistema establecido madrid gestiona una cultura estanca en la que la ciudadanía es un mero receptor pasivo de espectáculos comerciales globalizados donde no tiene opción a participar a crear

pueblos o ciudades ese es el modelo que nos quieren imponer desde madrid y a este paso y tristemente también desde el pnv con su no política cultural una no política cultural que está ahogando el sector en general a una gran velocidad

en particular está ahogando la pequeña cultura o cultura de base que es el modo de expresión de un país eta guk garbi dugu kultura propio barik ez dago herririk

gracias señora presidenta señora gorospe

sí estamos discutiendo también con el bono cultura de lo que nos importa hoy porque a mí lo que me importa es que el sector de la cultura está en las últimas es verdad

por eso la iniciativa que presenta hoy el grupo socialista el gobierno vasco

los presupuestos destruye y no crea explíquelo usted al sector porque no me ha respondido

porqué quita un producto que valora positivamente como el bono cultural que es imprescindible con la crisis que atraviesa el sector lo quita

no tienen política cultural destruyen y no crean respecto a la competencia para fijar el tipo

le recuerdo otra vez que los impuestos indirectos

del concierto económico aunque son impuesto concertados en cuanto a la recaudación está fuera el tipo para evitar producir desequilibrios

en el mismo estado y le digo la única forma coherente de que usted pida la competencia para el tipo

o de los impuestos indirectos en euskadi es que quiera que euskadi sea un estado independiente es lo que está pidiendo porque sino es una incoherencia lo que el concierto con muy buen criterio estableció el pacto es

de los tipos y de los impuestos directos no de los indirectos por la razón que le he dicho que es la tendencia que marcan las directivas europeas en toda la eurozona

culturales en su partido que lo que parece bien en bizkaia se hace independientemente de que el lehendakari retire el bono cultura en el gobierno vasco armonice usted eso preocúpese del sector y ya iremos hablando con tranquilidad

señor damborenea a veces defender como sea la trinchera es un perjuicio no ya digo personal sino para lo que uno defiende

que al partido popular le importa una higa la cultura ha dicho usted con toda claridad que

promover espectáculos promover la riqueza cultural eso es igual que hacer coches

la misma recaudación para sobrevivir ni la misma estructura está usted diciendo algo que no dicen ni partidos progresistas ni partidos conservadores

hacen lo contrario de lo que usted está diciendo que hay que hacer en toda europa hay un tipo reducido para el iva aplicado en la cultura y sin embargo ustedes llevan al tipo general

con lo que nos ha explicado la cultura es igual que hacer coches

de que es un derecho de los ciudadanos porque es una riqueza a parte de ser un sector económicamente e importante y por lo tanto

y usted defiéndala que los demás como el resto de europa defenderemos lo contrario que haya un tipo reducido para el iva respecto al acuerdo fiscal no haga más demagogia

está de acuerdo con él el acuerdo fiscal que da estabilidad y opciones de futuro en época de crisis a euskadi se basa en la lucha contra el fraude en

no razonables en que paguen más los que más tienen no incide contra cultura ni contra la clase media en general recauda para ayudar a aquellos que necesitan por tener situaciones especiales ser ayudados que son

o debería ser la cultura no juegue con los datos

y yo he dicho curándome en salud para que la verdad brille que la tendencia era a la baja en la actividad de artes escénicas de conciertos en estas actividades culturales

que están publicados por la sgae por el ministerio de hacienda de que

de manera desaforada y ha puesto contra las cuerdas al sector le ha dado la puntilla eso le estaba diciendo y en fin

si me permiten ha anunciado usted que se abstendrá su razonamiento ha ido en ese sentido

que en este caso como ustedes hacen habitualmente yo creo que han renunciado a hacer política la función de la política es solucionar los problemas de los ciudadanos y ustedes hacen dejación

los planteamientos políticos de una retórica a veces casi excesiva si me lo permite de las medidas necesarias para solucionar los problemas lo cual

vacíos que no cumplen la función de solucionar los problemas de los ciudadanos lamento decirle que en mi opinión la representación

por su renuncia a hacer política plena no solo discursos retóricos sino promover las actuaciones que favorecen a los ciudadanos como bajar

simplemente porque se reclama una instancia que no les gusta pero que es la que tiene la competencia negar la realidad es

que hay que bajar los impuestos le he recordado y me he limitado a parafrasear

y que en ese contexto en el contexto del discurso que ustedes están haciendo entiendo que votarán a favor de la iniciativa y que les parecerá bien bajar en este caso en concreto en el que la subida hace once meses fue de trece puntos y también

nos parecería razonable que del ocho por ciento que en su momento se aplicaba pudiera haber algún punto de subida en ningún caso

usted dice que es contradictorio apoyar esa iniciativa en el que en el tercer punto se pide que se solicite un único tipo de gravamen y el solicitar la capacidad normativa propia no es en absoluto contradictorio porque tener capacidad normativa propia no quiere decir que siempre tenga que ser distinto lo que se establezca sino que serán nuestros órganos los órganos competentes órganos forales quienes decidirán en cada caso y dependiendo de las circunstancias qué es lo que tienen que establecer no es en absoluto

no tenemos en cuestiones fiscales no tenemos nada que decirles probablemente en esto sería mucho más enriquecedor la aportación

lujo en los detalles se lo daría el pero quiere decirme cómo se consiguió la capacidad

en renta cómo se consiguió la capacidad normativa en renta a cambio de qué se consiguió la capacidad normativa quién la consiguió por qué si ustedes apoyan fuimos nosotros quienes tuvimos que cambiar cromos en el congreso

no la tenía euskadi pues la respuesta es porque en navarra

y euskadi siempre ha estado gobernado por los nacionalistas

esa es la razón por la que navarra tenía capacidad normativa y euskadi no porque no lo han conseguido ustedes respóndame a otra pregunta

el blindaje del concierto económico en el dos mil diez quién lo consiguió a cambio de qué y qué hicieron ustedes

señor damborenea de que usted que fue quien representó a este parlamento en el congreso de los diputados usted señor damborenea es un firme defensor del concierto económico pero no así su partido en madrid

esan behar no política cultural esaten dozuena

instalados en el no esa es vuestra posición instalados en el no

lo defendemos defendemos el concierto

tendrán la ocasión de demostrarlo porque ya que están gestionando el donostia dos mil dieciséis capital europea de la cultura vamos a ver si son capaces de presentar algo coherente como capital cultural de europa

todos los demás con los planteamientos que se están haciendo señor reyes al partido popular le importa un higo la cultura cómo se equipara con los coches

usted ha puesto como un ejemplo por el cual había que bonificar entre comillas a unos determinados empresarios privados que es que

usted ha hablado de mano de obra en su primera intervención y yo lo que le digo es que

y no le veo ni a usted ni a nadie planteándonos que como tienen mucha mano de obra

no valía en cualquier caso le voy a decir una cosa para que deje de hacer demagogia un poco sobre este tema españa es el país de europa que tiene el tipo del iva más alto para la cultura mentira

estamos por debajo de la media europea porque cultura además de los empresarios privados de teatros

es más lo que usted está planteando no llega ni al diez por ciento de lo que es la cultura en españa pero es que casualmente más del ochenta por ciento que por cierto son los libros está al cuatro por ciento que es tipo súper reducido súper reducido

por qué tiene tanto interés en un sector de empresarios tan concreto cuando le voy a recordar que por ejemplo en los teatros públicos

entonces esta preocupación suya de repente por un sector empresarial tan particular tan particular diciéndonos a los demás que es que la cultura nos importan muy poco y que hemos subido el tipo más alto de europa cuando no es verdad

lo cual es muy contradictorio pero muy contradictorio con tanta bajada

mire nosotros sí defendemos la cultura y además queremos que sea solvente

todos ellos todos ellos y evidentemente

y luego tenemos otros organismos mixtos de varias administraciones

de apoyar a la cultura y solo le voy a decir eso

ya ha dicho el gobierno que el año que viene va a plantear la bajada de impuestos señora gorospe ya lo ha dicho

dénos tiempo primero en fin tenemos que arreglar un poco en dos años está complicado arreglar el desaguisado que con sus votos

pero bueno dénos un poco más de tiempo y conseguiremos bajar los impuestos me habla usted que le explique lo de la capacidad normativa del irpf pues se lo voy a explicar

sí teníamos algo de capacidad normativa en el irpf básicamente en deducciones punto y en el año mil novecientos noventa y seis llegó

porque uno de los planteamientos era la reforma de la financiación de las comunidades de régimen común y entonces se habló de algo que era la corresponsabilidad fiscal y entonces esas comunidades autónomas por primera vez se les dio cierta capacidad fiscal en determinados impuestos entre ellos el irpf y dio la casualidad

todas las comunidades autónomas de españa tenían más capacidad en el irpf capacidad normativa

que el país vasco y ese debate lo tuvimos aquí y yo sé quién voto a favor y quién voto en contra y yo sé quién aquí voto en contra

con nosotros pero se sentaban aquí y yo sí me acuerdo quién voto en contra y yo sí me acuerdo por qué se modificó el concierto económico para eso

no hacía falta nada a cambio en este caso no señora gorospe en este caso no me dice el blindaje económico pues mire el blindaje económico sabe quién lo consiguió de verdad

dos veces a esto y no ha marcado ninguna de las dos constará en acta

la voluntad de votar a favor constará en acta en

hacia el mes de julio aproximadamente el departamento de educación publica la orden de ayudas por las que se financian los gastos destinados para la ejecución de

de gran reparación y mantenimiento de edificios de titularidad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la administración educativa es decir corresponden a los centros de titularidad municipal los centros de infantil y primaria

están destinadas única y exclusivamente para llevar a cabo esas obras de reparación y mantenimiento de edificios para la mejora de las instalaciones educativas ya que las obras propiamente de construcción de nuevos centros y otros centros educativos y otros elementos similares son llevados a cabo únicamente por el departamento de educación únicamente por el gobierno vasco

el coste de las obras se distribuye entre ambas administraciones recaen en una financiación compartida ayuntamientos gobierno vasco financiándose por parte del departamento de educación al sesenta por ciento

por los ayuntamientos el ayuntamiento hasta ahora debe adelantar el cien por ciento

mediante la subvención citada además

proyecto completo la adjudicación de las obras y la dirección facultativa de las mismas incluyendo el cumplimiento de la normativa al efecto sobre seguridad

la dotación presupuestaria para llevar a cabo obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal fue de diez millónes de euros estamos hablando para las obras del año dos mil doce concretamente el año pasado fueron ciento

los que solicitaron financiación para llevar a cabo doscientos noventa y dos obras en centros educativos del país vasco

que rondaba los ocho millónes y medio de euros aproximadamente lo correspondiente al sesenta por ciento de los presupuestado bien esta

ha permitido la optimización de los recursos públicos existentes y la rentabilización

realizadas por cada administración por este motivo el departamento de educación siempre ha estimado conveniente incentivar las actuaciones a desarrollar para la ejecución de obras de centros de titularidad municipal se consideró siempre oportuno incentivar

la acción de los ayuntamientos en este terreno para la mejora de la enseñanza general con objeto de acondicionar

en aras a una mayor calidad de la educación sin embargo en esta ocasión los ayuntamientos se enfrentan a una situación sin precedentes durante

a numerosos compromisos presupuestarios ante una escasez de fondos mermados seguramente por la difícil coyuntura económica que atravesamos pero lo que nos trae aquí lo que trae al grupo popular a presentar esta iniciativa

son muchos los ayuntamientos que ya han adelantado el cien por ciento del dinero que han ejecutado

en centros educativos a la espera de la publicación de la orden del gobierno y sin embargo todo parece indicar que en esta ocasión no van a poder contar con las ayudas previstas las ayudas para la mejora y acondicionamiento de esos centros con lo que todo ello implica

ya en el mes de noviembre finalizando el mes de noviembre y aún no sabemos nada de esta importante línea de subvenciones y que el año pasado supuso un apoyo

del país vasco consideramos y por eso traemos esta iniciativa prioritario instar al departamento de educación instar al gobierno vasco a que se comprometa

la orden de convocatoria de dichas subvenciones con el mismo importe al menos que en la convocatoria del año dos mil doce esos diez millónes de euros a los que hacíamos referencia anteriormente el pasado trece de septiembre la consejera en respuesta a una pregunta escrita del grupo socialista

de tramitar una nueva convocatoria que pudiera abarcar las actuaciones acometidas desde la finalización de la anterior convocatoria hasta agosto de dos mil catorce destinando para ello la cantidad que se detallará en los presupuestos previstos en el dos mil catorce eso decía la consejera en su respuesta del trece de septiembre

convocar una orden para dar satisfacción a las obras del dos mil trece y del dos mil catorce o de buena parte del dos mil catorce y resulta que una vez conocidos los presupuestos de la comunidad autónoma vasca para ese año para el próximo año finalmente vemos que la partida destinada a obras de gran reparación en centros de titularidad

millónes de euros una reducción del cuarenta por ciento sobre lo presupuestado en dos mil doce que además pretende extenderse

por supuesto que compartimos que la nueva convocatoria debe abarcar

más las del siguiente como no podía ser de otra forma pero

si bien estamos de acuerdo en ese aspecto desde luego consideramos que la cantidad de seis millónes de euros yo creo que a la vista de todos está que la cantidad de seis millónes de euros va

claramente insuficiente para afrontar las obras realizadas en dicho período sobre todo teniendo en cuenta como les decía antes que la dotación ya en dos mil doce era de diez millónes y que para todo este período doble

solo seis millónes de euros por ello consideramos que dicha orden de ayudas no solo debe comprender las obras realizadas desde enero de dos mil trece sino que además el importe consignado de estas ayudas tiene que ser al menos igual o superior al previsto ya en el presupuesto de dos mil doce en definitiva

que tradicionalmente ha venido comprometiendo el gobierno vasco con los ayuntamientos para la reparación y mantenimiento de esos

por una educación de calidad y garantizando desde luego las ayudas y el apoyo necesario para la mejora continua

además y para finalizar hemos firmado una enmienda de transacción con el grupo

además de lo explicado de completar nuestra iniciativa incorporando la petición al gobierno

de conservación de esos centros educativos de titularidad municipal un estudio que nos tiene que llevar a conocer las necesidades y de acuerdo con las conclusiones de ese estudio también solicitamos la presentación de un plan

de una planificación de lo que tienen que ser las inversiones en obras

y de mejora de los centros de titularidad municipal previstas y en previsión de ese estudio previstas para el conjunto de la legislatura

que creo que completaba la propuesta inicial y que la sometemos a su consideración en este caso para respaldar de verdad y de manera efectiva con recursos económicos el empeño y el esfuerzo que están haciendo también los ayuntamientos

la iniciativa original planteada por el grupo popular nosotros presentamos una enmienda de totalidad que lo que pretendía hacer era completar esa iniciativa original completar y mejorarla esta enmienda de totalidad de upyd tenía dos puntos en primer lugar se proponía instar al gobierno a destinar como mínimo la misma partida que en el presupuesto prorrogado de dos mil trece en grandes inversiones destinadas a centros docentes y a presentar en el plazo de tres meses un plan de inversiones

de titularidad municipal durante la presente legislatura y en el segundo punto proponíamos instar al gobierno a presentar en el plazo de seis meses un estudio

a fin de que se analice la necesidad exacta de recursos públicos para la conservación de estos centros garantizando así la calidad educativa de los mismos

todo esto se ha recogido en la enmienda transaccional que hemos firmado con el grupo popular por ello

que una mayoría de grupos voten a favor de esta transaccional apoyamos que el gobierno sufrague las inversiones que haya que hacer en esos edificios porque es quien realmente tiene la competencia educativa y por mucho que la propiedad de los centros sea municipal al final son edificios destinados a tareas educativas y debe ser

tanto en lo que se refiere a la infraestructura como en la dotación de medios por lo tanto es el ejecutivo el que tiene que hacer ese esfuerzo económico para que sean lugares con unas condiciones dignas y que los ayuntamientos no se vean obligados a destinar más recursos o a no recuperarlos a esos fines supliendo

que educación se preocupa o debería preocuparse de que estos edificios estén en buenas condiciones lo mismo debería ocurrir con los que sin ser de su propiedad están destinados

educativas en fin esta es la enmienda de transacción que nosotros hemos firmado nos parece que es una enmienda razonable esperamos que el gobierno cumpla este mandato parlamentario si es que finalmente se aprueba nosotros esperamos que efectivamente

mayoritario de los parlamentarios gracias eskerrik asko maneiro jauna